osasuna hezkuntza eta ekonomiari eta enplegu sustapenari bultzada ematea al menos estas son las prioridades de este gobierno es decir que los recursos asignados a las instituciones comunes los recursos disponibles se destinen prioritariamente a lo que se llama gasto social aunque nosotros preferimos denominarlo inversión social

no obstante no podemos dejar de prestar atención a estas infraestructuras físicas también hay que invertir en ellas

en materia ferroviaria la apuesta de este gobierno vasco por el desarrollo y el cumplimiento del objetivo europeo de construir una nueva red de alta velocidad ferroviaria en el denominado eje atlántico también es evidente señorías

pero además de la red de alta velocidad también hay que prestar atención a la red ferroviaria titularidad de la comunidad autónoma no es conveniente dejar desatendida nuestra red propia no es conveniente descuidar el mantenimiento y la mejora de la misma

una red que sirve para dar servicio a miles de ciudadanos en sus desplazamientos cotidianos por eso le preguntamos señora consejera qué actuaciones realiza el gobierno para mantener y desarrollar la denominada red ferroviaria propia de la comunidad autónoma de euskadi como son las líneas ferroviarias

donostia irún metro y los tranvías de vitoria gasteiz y bilbao

milaka euskal herritar garraiatzen ditu en el caso de álava gestionamos directamente el tranvía de la capital pero además hemos conseguido que el ministerio

trabajamos también en la progresiva consecución del billete único ya activo entre ermua y elgoibar y el año próximo extendido a los tranvías de bilbao y vitoria gasteiz

precisamente el gobierno vasco está presente en las reuniones de trabajo sobre movilidad ferroviaria de la eurorregión aquitania euskadi

en la conexión de los servicios de euskotren y su metro de donostialdea topo en la estación de hendaya con los de ter y sncf hasta baiona

pretendemos que sea impecable coincidiendo horarios en esa transferencia para que las personas que utilicen en uno y otro sentido metro de donostialdea y ter

en definitiva la red ferroviaria vasca gestionada por euskotren es una de nuestras prioridades para conseguir un transporte sostenible

por ello le dedicamos una atención preferente en cuanto a la planificación gestión y mantenimiento eskerrik asko besterik ez eskerrik asko

hiru urtetarako en plan de choque por el empleo de marzo del año pasado las aportaciones recibidas la experiencia

unidos al acuerdo y unidos también a los recursos con que nace esta iniciativa son la garantía para cumplir las iniciativas comprometidas estas son las razones que nos permiten defender los objetivos planteados para el programa marco por el empleo y la reactivación económica con el que vamos a invertir seis mil cuatrocientos setenta y cinco millónes de euros en tres años

hace diez meses señora arrondo pusimos en marcha un plan de choque ahora sí con el partido socialista hemos aprobado un nuevo programa marco nacido con un consenso y con un respaldo

señora arrondo remitió el documento para su contraste y mejora remitió el documento para su contraste y mejora ustedes han tenido la oportunidad

ustedes han tenido esa oportunidad de realizar aportaciones y propuestas

su estrategia ha sido hasta el momento el no y yo no me voy a enredar en su estrategia negativa del no permanente beraz ni ez nahiz orain arteko erakutsitako estrategia horretan

lo que les pido por lo tanto es que sumen y se sumen a este programa marco por el empleo y la reactivación económica les pido una actitud propositiva y positiva

en la que hasta ahora han estado instalados y si compartimos el objetivo podemos compartir las iniciativas que este gobierno ha comprometido y está poniendo en marcha

dos afirmaciones en el curso de dos años la primera el partido entre el athletic y el barcelona se debe suspender y celebrarse a puerta cerrada

entonces presidenta de la comunidad de madrid en mayo de dos mil doce

y la segunda si la selección española juega en san mamés

y de seguridad ciudadana hecha por el diputado general de bizkaia josé luís bilbao

decida sobre las sedes de la eurocopa dos mil veinte dos frases las dos lamentables dos frases que los socialistas repudiamos dos frases que son otros tantos juegos peligrosos de provocación puestos en marcha por quienes actúan

y el lehendakari qué piensa de esto repudia las dos frases por igual le recuerdo

son una provocación y las de josé luís bilbao

le parecen lo mismo o las comparte eskerrik asko pastor jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor pastor me habla usted de varias declaraciones yo le voy a hablar de la más importante

la declaración de interés así denominada declaración de interés remitida por el athletic club a la federación española de fútbol el día dos de septiembre del año pasado

bilbao declara su interés en acoger organizar y celebrar partidos correspondientes a la eurocopa dos mil veinte como usted comprenderá voy a responder

en el año dos mil doce pero debe saber usted que el hecho objetivo el hecho relevante es que esta declaración de interés está avalada por las tres instituciones públicas y el athletic club esta declaración de interés fue remitida por cuatro ciudades candidatas valencia barcelona madrid y bilbao

y madrid pasaron el primer corte espero que hubiera ayudado a ello el contar con todo el respaldo institucional necesario del ayuntamiento

además del athletic club somos participes de un mismo objetivo

pero creo que había dos bilbaos en esa declaración uno es la declaración institucional de la ciudad de bilbao pidiendo acoger la

uefa como sede de la uefa y otra son las declaraciones del señor bilbao

porque quiero creer que esas declaraciones nunca estarían en su boca y estoy convencido además de que probablemente no las comparte por lo tanto le pido que tenga la valentía de decirlo

nos parece de extraordinaria gravedad y desde luego más propias de la liga norte italiana o de la extrema derecha populista

y además son expresiones que llevadas al extremo harían imposible por ejemplo que jugarán en bilbao equipos como el real madrid al que tuvimos ocasión de ver hace poco

de seguridad según el señor bilbao o cree usted que las palabras del diputado general son el mejor salvoconducto para que los aficionados vascos se desplacen a la capital de españa

usted es el máximo representante institucional de este país por eso nos dirigimos a usted y alguna reflexión tendría que aportar cuando hay quienes dentro de su partido aprovechan su posición para echar gasolina al fuego de la crispación y de las emociones patrioteras

del pnv por el propio alcalde de bilbao y por el ayuntamiento a instancias por cierto del grupo socialista porque sabemos lo que desean nuestros comerciantes

pueda ser sede de la eurocopa como lo fue de congresos médicos como fue también una etapa de la vuelta ciclista a españa que todo el mundo parece que coincide en que tuvo un éxito importante tiene hoy la ocasión señor urkullu de decir que lo que necesita este país

y no enfrentarse por pasiones identitarias que otros alimentan irresponsablemente creo que hoy tiene usted una oportunidad aquí en este parlamento de decir esto a la sociedad vasca señor lehendakari y hacer un ejercicio de pedagogía democrática muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor pastor eurocopa dos mil veinte candidatura de bilbao para que sea

que las instituciones públicas estamos comprometidas estamos de acuerdo el ayuntamiento la diputación y el gobierno hemos declarado que la elección de bilbao como sede redundaría en beneficio de la ciudad de bizkaia

las instituciones vascas hemos declarado nuestro interés también en que la selección vasca pueda tener la oportunidad de participar en esta eurocopa

todas las instituciones sabemos evidentemente que un evento de estas características va a requerir en sí mismo unas altas medidas de seguridad

para conseguir la eurocopa dos mil veinte y para garantizar en el caso de que bilbao sea sede las mejores condiciones de seguridad para visitantes y residentes sean cuales sean las selecciones que disputen sus encuentros

son los hechos señor pastor las tres instituciones hemos trabajado juntas por ejemplo para que el mundial de baloncesto se celebre este año en euskadi hemos compartido un objetivo común y lo hemos conseguido y ahora compartimos

queremos que bilbao sea sede de la eurocopa dos mil veinte y queremos que euskadi pueda participar compitiendo oficialmente ambos objetivos son posibles y ambos objetivos son compatibles le diría más ambos objetivos

podría multiplicar mucho más el éxito que todos perseguimos eskerrik asko

meses del año dos mil trece ha mantenido reuniones discretas

políticas que nos puedan parecer o merecer esos encuentros sí que nos parece que llama la atención que el lehendakari

dentro de la ponencia creada en el parlamento vasco por eso le preguntamos

y de su intercambio de documentos con dirigente de esta formación fuera del ámbito parlamentario desconfianza

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señora quiroga sobre lo secreto y lo discreto ya

y creo que no será por mí lo de la discreción que se pueda vulnerar pero en todo caso también seguiremos teniendo este tipo de acusaciones en todo caso

que tengo confianza plena en la ponencia de paz y convivencia trabajo y voy a seguir trabajando para que sea el foro en que nos sentemos todos los grupos políticos grupos parlamentarios para avanzar juntos en base al principio del contenido conocido

que fue aprobado en la anterior legislatura y ratificado en la presente legislatura todas las reuniones que he mantenido públicas y privadas con partidos y grupos parlamentarios con agentes sociales todas

las reuniones dentro del ámbito parlamentario demuestran mi confianza en la ponencia y las reuniones fuera de este ámbito fuera de este ámbito también o cree usted

es lo contrario el objetivo es sumar no dejar a nadie al margen construir el máximo consenso estoy cumpliendo con mi palabra

contribuir a generar confianza y superar obstáculos de forma que se pueda desplegar el potencial democrático de diálogo y acuerdo que la ponencia representa

se han planteado en base a principios recogidos en el suelo ético aprobados por este parlamento o recogidos en el plan de paz y convivencia principios escritos

reconocimiento de todas las víctimas desarrollo de soluciones legales en la política penitenciaria

usted sabe señora quiroga que hemos planteado estos principios en todo momento eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

lo décimos por responsabilidad política y también por eficacia política todos los temas y cuestiones que afecten a paz y convivencia porque así lo decidió este parlamento se traten en la ponencia que para eso se creó esta frase no es mía lehendakari esta frase es de su portavoz del portavoz del grupo parlamentario nacionalistas vascos el señor

hace poco más de dos meses hoy sabemos

a la defendida por su grupo parlamentario resulta chocante que el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco apelen a la ponencia de paz como marco delimitado para las políticas relativas al fin del terrorismo y al mismo tiempo prescinda de ella para de tapadillo intercambiar documentos con la izquierda abertzale

su propia contradicción certifica lo evidente una evidencia en la que coincidimos

pero los hechos y su actuación política le delatan

la ineficacia de un instrumento que solo contribuye a tapar las vergüenzas democráticas de bildu sin ningún recorrido democrático posible condenado a encallarse una vez más en la piedra de siempre un instrumento para esconder la resistencia voluntaria

a rechazar con claridad y sin rodeos cuarenta años de terrorismo y a reconocer el enorme daño provocado a miles de personas inocentes con el objetivo de quitarse de encima la responsabilidad y las obligaciones políticas este es un momento lehendakari para hablar claro para no esconder estas vergüenzas democráticas para airearlas y responderlas este es un momento

cuando alguien pretende sumarse a la construcción democrática de euskadi desde la legitimación y la justificación del terrorismo de eta porque una cosa y la otra son incompatibles no ganamos nada lehendakari escondiendo esa realidad en una ponencia parlamentaria al contrario perdemos mucho

desde la deslegitimación del terrorismo desde el rechazo a eta y desde el reconocimiento a sus víctimas no empieza desde una ponencia a puerta cerrada que pretende condicionar el camino democrático de euskadi a cambios en la política penitenciaria del gobierno de españa

claro lehendakari yo le pido que trabaje por deslegitimar esa etapa

de españa que no vaya de la mano de los que tanto daño han provocado y que de verdad construyamos una democracia plena y libre en euskadi esa es su responsabilidad

y que no esté tanto en el cálculo político eskerrik asko quiroga andrea

hemos hablado con sortu y con todas las formaciones políticas

nos encontramos por ejemplo entre el veinte de septiembre y el veintiséis de noviembre del año pasado en el plazo de presentación de aportaciones al plan de paz y convivencia previa a su aprobación dos meses de reuniones con grupos políticos parlamentarios y sociales

las reuniones con su grupo parlamentario tuvieron lugar los días veintiocho de octubre siete de noviembre veintiuno de noviembre y también he mantenido encuentros con usted señora quiroga mire

documentos que yo haya entregado a la izquierda abertzale si es que he entregado alguno yo a la izquierda abertzale los tiene el presidente del gobierno español antes y los tiene usted

usted hablamos con el partido popular y también con todos los grupos también con la izquierda abertzale señora quiroga sí me obliga usted a tener que decir estas cosas

lo reprochable sería que no lo hubiéramos hecho o cómo plantea usted resolver los problemas si no es hablando si no es dialogando si no buscamos puntos de encuentro lo importante de estas reuniones es el resultado final siendo honesto con el plan de paz y convivencia

este plan es nuestro guión es claro es transparente es conocido y lo vamos a cumplir

y este compromiso ante la sociedad le invito a avanzar conjuntamente no me pida a mí confianza en la ponencia a la que tanto se ha referido en su intervención
y de la que usted no participa es usted quien tiene que demostrar confianza eskerrik asko

consejera esta es una pregunta constructiva constructiva como lo fue la propia declaración institucional que se aprobó ayer en este parlamento

a la cuestión y constructiva también como fue la presencia en la comisión correspondiente de los propios trabajadores de edesa es una pregunta por lo tanto que quiere ayudar

el mejor futuro posible porque esto sería positivo para el conjunto de la sociedad la pregunta es si ha analizado el gobierno vasco el plan de viabilidad presentado

si va a dar respuesta pública al mismo si esta respuesta va a ser inminente o se va a producir en los próximos días

si van ustedes a darle el apoyo los trabajadores ciertamente tienen dudas sobre la cuestión creo que haría falta un posicionamiento del gobierno vasco creo que es un plan de viabilidad elaborado por los propios trabajadores que puede considerarse riguroso serio y bien planteado y bien trabajado que ha sido entregado al propio gobierno

a la diputación foral de gipuzkoa a la diputación foral de bizkaia parlamento creo que efectivamente este plan es serio es riguroso y merece ser tenido en cuenta más allá de que el propio gobierno pueda introducir las mejoras que considere los trabajadores están esperando la respuesta del gobierno y de mil doscientos el tiempo

edesa puede morir por lo tanto yo le pido la máxima concreción posible para que efectivamente diga si ha analizado este plan de viabilidad cómo lo ve y si efectivamente podría futuro ya digo que este plan ha sido percibido en general como positivo por los grupos parlamentarios y por distintas diputaciones el asunto a día de hoy está sin resolver cuánto tiempo se tarda en analizar un plan de viabilidad esa es la pregunta da la sensación de que el gobierno vasco y mil doscientos se mantienen

como mirándose de reojo a ver quién habla primero sin querer posicionarse claramente sobre la cuestión y este mirarse de reojo puede tener

que no sea por la inacción por la insensibilidad

del gobierno vasco creo que esto es lo más importante que yo quiero decir que no sea porque el gobierno vasco no hizo todo lo que podía hacer para ayudar a esta empresa ya digo siempre con el máximo rigor con la máxima seriedad esto lo exigimos nosotros por supuesto que sí pero también con diligencia
esa es la pregunta que yo le hago gracias eskerrik asko maneiro jauna

le agradezco señor maneiro el espíritu constructivo de la pregunta

y analizado el plan de viabilidad presentado por edesa para el conjunto de la línea de confort de fagor electrodomésticos para el conjunto para edesa y para geiser

bajo tres premisas en primer lugar la necesidad de un plan de viabilidad riguroso en segundo lugar la necesidad de que existan accionistas empresarios

y en tercer lugar el acompañamiento necesario por parte del gobierno y el resto de instituciones del gobierno en este caso que es lo que nos corresponde

en primer lugar que el plan de viabilidad desde luego está bien presentado pero

dado que nos encontramos ante una primera aproximación a un plan cuyas variables clave dependen de terceras todavía

en cuanto al segundo elemento es el que hay que despejar la posición de la propia corporación puesto que en el propio plan aparece como el único inversor

este plan de viabilidad a futuro además de los propios trabajadores resulta imprescindible despejar esa cuestión puesto que no hay ningún otro inversor privado y además

requisitos imprescindibles por ello las instituciones estamos reclamando insistentemente a la corporación insisto porque aparece como único inversor

a este respecto y tengo que señalarle que nosotros como gobierno

a los propios trabajadores de edesa de forma privada evidentemente porque creemos que todavía hay que trabajar muchos aspectos la pasada semana el martes

privadamente es cierto porque creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer hay que despejar todavía muchas dudas y señalarle también que tenemos que considerar dos aspectos adicionales

y en segundo lugar que tenemos que ser muy cuidadosos con todas las leyes de la competencia y del propio marco europeo que nos permiten dar unas determinadas ayudas
y trabajar con unas determinadas empresas eskerrik asko tapia anderea maneiro jauna zurea da hitza

me alegra saber que el martes tuvieron conocimiento expreso por parte del gobierno yo le quiero decir que su actitud y su posicionamiento pueden ser claves creo que es importante

ayudar a salvar esta empresa y garantizar su futuro ya digo no depende solo del gobierno pero el gobierno puede ayudar

les pido que actúen de manera responsable de manera seria pero también de manera diligente edesa y miles de personas están esperando una respuesta y evidentemente el tiempo se acaba y la propia corporación debería posicionarse ya

ciertamente importante gracias consejera eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

está siempre al lado de todas esas empresas que requieren una reestructuración y una puesta en marcha de un plan de viabilidad lo está en este caso y lo está siempre de la forma más discreta posible porque se trata de elementos muy importantes hacen referencia a personas en definitiva personas que están en riesgo de perder su empleo y lo vamos a seguir haciendo con la máxima diligencia y nuestra máxima voluntad

en este caso además señalar que edesa geiser es un ámbito importante

que estamos trabajando con los administradores concursales que requieren no hay que olvidarse de una oferta muy concreta puesto que estamos en este plazo de

con esos tres puntos de los que hablábamos un plan de viabilidad con inversiones a futuro y con desarrollo de futuro accionistas quién va a poner el dinero en qué condiciones privados
de ayuda y sobre todo en qué plazos compitiendo con otras ofertas que existen ahí estamos trabajando y lo vamos a continuar haciendo eskerrik asko eskerrik asko

por imperativo legal patriarkatuaren kiratsa

el gobierno de españa aprobó el pasado mes de diciembre el anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de las mujeres actualmente

se encuentra en su tramitación ordinaria en cortes generales más concretamente en sus trámites preliminares este ante proyecto que de finalizar el proceso parlamentario

se convertiría en ley orgánica modificaría por tanto la actual legislación respecto a la interrupción voluntaria del embarazo pero en nuestra opinión es todavía prematuro pronunciarse sobre cuál será el resultado final de este proceso y aunque podamos especular

nos indica que este es un debate fundamentalmente ético

y vigente legislación estamos convencidos que garantizan

en el ámbito de la salud sexual y reproductiva velando también

un clima de consenso similar al de las sociedades europeas de nuestro entorno

actualmente no había debate ni necesidad de cambiar

vigente que desde este gobierno defendemos y defenderemos la ética de la vida a través de una legislación que concilie y respete

de las mujeres y también la seguridad jurídica de mujeres y profesionales sanitarios implicados y también transmitirle que el margen de maniobra del gobierno vasco en este terreno legislativo es como seguramente conocen limitado

es legislación básica y por lo tanto si se aprobará será aplicable en todo el estado de aprobarse el anteproyecto en trámite la ley de plazos actualmente en vigor y a la que les recuerdo el partido nacionalista vasco

eteteko aukera errespetatzen da de todas formas señora etxebarria a pesar de que el papel lo aguanta todo me gustaría dejar claro nuestra posición

en diversas ocasiones varios miembros de este gobierno es un tema que entendemos despierta una gran sensibilidad y es importante para la sociedad en general y para las mujeres en particular

es trabajar conjuntamente también con ustedes dentro de los márgenes que permite la legislación y nuestra capacidad de autogobierno para defender la ética de la vida

y los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito sexual y reproductivo gai honi buruz

entzungo duzunik nire ahotik este gobierno a través de varios de sus miembros ha manifestado públicamente

un paso atrás francamente incomprensible porque la ley actualmente en vigor cuenta con un amplio respaldo social también hemos dicho y lo reafirmamos que el gobierno de españa actúa en contra de la postura de la inmensa mayoría de los grupos políticos y reabre una cuestión que estaba socialmente encauzada y resuelta estamos ante una decisión que entendemos partidista

de gran calado social esta forma de actuar para nosotros no es recomendable jaurlaritzak

el grupo parlamentario nacionalistas vascos votó el pasado octubre

en pro de una maternidad libremente decidida posicionándose también en contra del entonces anuncio de reforma de la ley en esta cuestión como en tantas otras la realidad ayuda a comprender y dimensionar la problemática existente desde que entro en vigor la legislación

el número de interrupciones voluntarias del embarazo ha disminuido ligeramente y la mayoría se dan en el plazo de las primeras catorce semanas

aunque resulta obvio merece la pena recordar que nadie obliga a una mujer a abortar pudiendo con una ley de plazos como la vigente garantizar

actúe de acuerdo al dictado de sus convicciones éticas los datos también reflejan que la interrupción voluntaria del embarazo

y sigue siendo una realidad hoy la forma de abordar este dilema ético para nosotros no es un cambio en la legislación

o a países de nuestro entorno con leyes de plazos como usted ha dicho sino una educación sexual adecuada y el acceso correcto

de contracepción desde esta orientación nuestro posicionamiento a favor del mantenimiento de la legislación actualmente vigente está fundamentado en realidades tangibles
y también por supuesto en nuestro ideario ético eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

creo que como he mantenido en la primera parte de mi intervención nuestra posición

estamos con el mantenimiento de la actual legislación de plazos

los derechos de las partes implicadas y así lo vamos a defender nos preocupa

y estamos anclados a la realidad y lo vamos a trabajar la realidad

las políticas de los sucesivos gobiernos vascos han trabajado en educación sexual y en valores en políticas de planificación familiar en información y en acceso a la anticoncepción intentando siempre prevenir estas situaciones

es un fracaso social y un trauma seguro personal para quien lo sufre también desde emakunde se lleva años trabajando políticas

en un plano de igualdad incluyendo los campos afectivo y sexual y para mejorar las condiciones de vida conciliando mejor la vida personal y laboral

y la planificación familiar son las políticas más eficaces para prevenir la interrupción voluntario del embarazo y en la que vamos a continuar poniendo todos nuestro empeño

le puedo asegurar que vamos a trabajar la realidad y vamos a intentar desde nuestras competencias y desde nuestra responsabilidad también en las cortes

anterior pondremos todo nuestro compromiso y esfuerzo para salvar nuestras competencias y garantizar los derechos y las concepciones éticas de todas las personas

me responderá supongo el pasado día veintiséis de septiembre el parlamento vasco aprobó varias propuestas de resolución relativas a actuaciones contra el fraude fiscal y la elusión fiscal también aprobó distintas propuestas de resolución en relación

la propuesta de resolución relativa a actuaciones a llevar a cabo para luchar contra el fraude fiscal planteaba la necesaria creación de la comisión de lucha contra el fraude fiscal

del órgano de coordinación tributaria esta propuesta de resolución aprobada por el parlamento explicitaba

en modo en que las decisiones de esta comisión se adoptarán

y la periodicidad de sus reuniones ordinarias obviamente esto es consecuencia del entramado institucional vasco que tenemos no puede el gobierno vasco actual elaborar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal sin más

diputaciones tiene que crear una comisión al efecto tiene que destinar todo un mes para crear esta comisión

tiene que tener en cuenta también los diferentes planes que realiza cada diputación y como consecuencia de todo ello evidentemente resulta que estamos en febrero del dos mil catorce

un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal esta es la realidad a pesar de que llevamos años y años discutiendo sobre la cuestión unos cuantos años ya esta propuesta de resolución relativa a actuaciones contra el fraude fiscal planteaba la necesidad de formalizar un sistema estable y recíproco de intercambio de información

incluyendo la interconexión de las bases de datos tributarias consecuencia también

que tenemos consecuencia también de que tengamos tres diputaciones de que tengamos cuatro parlamentos de que las competencias estén

en las juntas generales de los territorios históricos y en las propias diputaciones como consecuencia de esto tenemos que poner en marcha toda esta serie de artilugios para

fiscal además se plantean las acciones oportunas para mejorar y completar el intercambio de información con trascendencia tributaria entre todas las instituciones competentes que son muchas en la materia con el fin de implementar la comunicación e interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias nosotros señor consejero

a esto que le digo es decir a la creación de una comisión de lucha contra el fraude fiscal y la elaboración de un plan conjunto de lucha contra el fraude en el seno del órgano de coordinación

año dos mil catorce estamos en febrero del año dos mil catorce y

defendiendo la apuesta en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal desde dos mil nueve desde dos mil nueve venimos defendiendo en marcha de un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal han pasado cuatro años y todavía seguimos esperando

se ponga en marcha para el objetivo de intentar reducir este fraude a la mínima expresión sabemos que es un problema gravísimo en euskadi podemos estar hablando de dos mil quinientos millónes de euros anuales que

el gobierno no hace todo lo posible para luchar contra el fraude por lo tanto esto es ciertamente decepcionante

cinco años después todavía sigamos hablando de esta cuestión y todavía no se haya puesto en marcha no sé si esta comisión que parece que sí pero

este plan conjunto de lucha contra el fraude es ciertamente una cosa de locos que no seamos capaces como consecuencia de que el gobierno no ha querido como consecuencia de que el partido nacionalista vasco no ha querido como consecuencia de que otros

y como consecuencia también del enrevesado y absurdo entramado institucional que tenemos que no hayamos sido capaces de poner en marcha este plan que es absolutamente indispensable para luchar mejor contra el fraude ya digo desde el año dos mil nueve desde el año dos mil nueve upyd viene defendiendo y ya defendía en aquel año no solamente mejores mecanismos

la propia reforma del sistema tributario vasco recordamos perfectamente las discusiones sobre la cuestión el partido nacionalista vasco se negaba

una y otra vez a modificar el sistema tributario vasco porque decía que era el apropiado reiteradamente el partido nacionalista vasco cuando estaba en la oposición se negaba a modificar el sistema tributario vasco más allá de pequeñas pinceladas menores

y pudieran destinarse a implementar a impulsar políticas sociales recordamos perfectamente ese boicot permanente del partido nacionalista vasco a reformar

del sistema tributario vasco recordamos también perfectamente la negativa de los partidos foralistas a plantear

de las competencias fiscales de las juntas generales de los territorios históricos al parlamento vasco para garantizar la mayor igualdad posible lo recordamos tanto es así que a día de hoy

del que ustedes hacen permanentemente gala y que perjudica clarísimamente los intereses de los ciudadanos vascos recordamos por lo tanto la negativa del partido nacionalista vasco a impulsar esa reforma fiscal para poder tener un sistema tributario

a trasladar las competencias fiscales de las juntas a este parlamento recordamos también la negativa del partido nacionalista vasco

nuevas medidas de lucha contra el fraude el partido nacionalista vasco se negó durante años dijo que no había que modificar nada que las cosas estaban haciendo bien

excesivamente importante y que los vascos éramos gentes seria y rigurosa que pagaba como correspondía

nuestros impuestos negaba por lo tanto permanentemente ese gran problema que sigue existiendo en euskadi que es el fraude fiscal lo recordamos perfectamente

ustedes nos decían que no teníamos que traer este tipo de iniciativas a esta cámara porque no éramos competentes en fin pasaron los meses y los años y hubo una mayoría y una minoría parlamentaria distintas se configuró una mayoría y una minoría parlamentaria distinta y a partir de ahí

para asumir determinados planteamientos en relación a la reforma fiscal en relación a la lucha contra el fraude finalmente como digo el veintiséis de septiembre se aprobaron esas resoluciones y se aprobó en concreto esa resolución

de upyd hace aproximadamente mes y medio se le preguntaba por esta cuestión a usted mismo y usted recordaba que el pleno del parlamento vasco del veintiséis

aprobó esa resolución que pedía que el gobierno y las diputaciones conformaran una comisión de lucha contra el fraude el veintiséis de septiembre se aprobó

en el mes de octubre se crea esa comisión es decir todo el mes de octubre para crear esa comisión

las tres diputaciones forales y el gobierno vasco decía usted han ido nombrando a los miembros de la comisión de lucha contra el fraude fiscal

que el cometido fundamental era la elaboración de un plan de lucha contra el fraude fiscal y los miembros de la comisión de lucha contra el fraude están en este momento en la labor de realizar los cometidos que le asignó esta resolución institucional era ya mediados del mes de diciembre el parlamento también recordaba usted instó a las diputaciones forales para que en el marco de la cooperación interinstitucional acordaran entre ellas la realización mediante convenios de cooperación

de datos tributarios otra vez las diputaciones decía usted están trabajando para acordar y formalizar los convenios de colaboración

para que lleguen a buen fin los acuerdos y el tiempo pasa como decía la canción y ustedes a ritmo de caracol también

institucional que tenemos en fin señor consejero cómo está la cuestión cuatro años y medio después de que se le pidiera upyd al gobierno anterior
el plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal está o no está gracias eskerrik asko maneiro jauna

con todo el respeto no sé si reír o llorar es ciertamente sorprendente la respuesta que usted ha dado porque básicamente lo que ha venido a decir y lo que ha dicho es que está todo el mundo trabajando y los frutos se verán en breve todo el mundo está trabajando y los frutos se verán en breve pero a día de hoy no tenemos una cosa ni la otra

de los datos porque todo el mundo está trabajando y los meses pasan y los años pasan y evidentemente

un dedo para luchar más y mejor contra el fraude fiscal y es evidente que este gobierno tampoco quiere mover un dedo para luchar más y mejor contra el fraude fiscal esta es la conclusión dos conclusiones básicamente que este gobierno no quiere mover un dedo para luchar más y mejor contra el fraude fiscal y que el entramado institucional que tenemos imposibilita

o al menos impide que haya una mejora de esa lucha contra el fraude fiscal a los datos me remito y a su respuesta me remito que ha sido la misma respuesta que hace mes y medio dio en este parlamento a un parlamentario

es ciertamente sorprendente aunque no tanto porque conocemos las dificultades que este entramado institucional pone a los ciudadanos pero es ciertamente

hablando años en nuestro caso reclamando sobre un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y que sigan pasando los meses y siga sin ponerse

meses de diálogo entre distintos partidos políticos pleno monográfico de fiscalidad del pasado día veintiséis de septiembre aprobación de las resoluciones

en el mes de octubre se creó la comisión es decir un mes entero para crear la comisión otro mes entero para que las diputaciones forales y el gobierno

otro mes entero para que puedan reunirse y hablen exactamente no sabemos de qué otro mes entero estamos ya en enero para que sigan hablando

se ponen de acuerdo y son capaces de articular el mejor plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y el mejor sistema de intercambio de información de datos el tiempo sigue pasando esto sin ir más lejos entre otras cuestiones demuestra que el entramado institucional

upyd es un auténtico disparate que perjudica a los ciudadanos vascos perjudica clarísimamente a los ciudadanos vasco y esto hay que cambiarlo y hay que cambiar la lth

crear un plan conjunto de lucha contra el fraude pasen

de ponerse de acuerdo y de ponerlo en marcha en fin

las dos conclusiones que nosotros sacamos usted ha dado básicamente la misma respuesta que otro parlamentario de otro grupo parlamentario dio mes y medio la misma respuesta una descripción de lo que se ha hecho de la propuesta de resolución de que se ha creado la comisión de que se han elegido los técnicos

esos frutos nosotros en todo caso evidentemente vamos a plantear una moción para exigir al gobierno la puesta en marcha de este plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal

para modificar claramente este entramado que ciertamente es un obstáculo

para mejorar la vida de los ciudadanos vascos nada más y muchas gracias eskerrik asko

concejales cero junteros solo un parlamentario un proyecto político presentado a la sociedad con un parlamentario bueno reír o llorar yo no voy a hacer calificaciones ahí están los resultados

cero concejales en elecciones municipales cero junteros en elecciones forales un parlamentario de setenta y cinco reír o llorar usted verá las consecuencias pero la ciudadanía vasca responde a su proyecto político y a su modelo institucional

en cuanto al fondo del asunto yo también le tengo que replicar

yo no me voy a subrogar en la responsabilidad de los diputados de hacienda de las tres diputaciones que anualmente comparecen dos veces en los respectivos parlamentos en las juntas generales

inicialmente a principios de año y a mediados de año del balance del año anterior de las medidas y los efectos que ha tenido la lucha contra el fraude

el fraude que pueda existir las instituciones están muy comprometidas todas las instituciones

nuestro sistema institucional para luchar contra el fraude fiscal yo tengo una valoración completamente distinta a la que usted dice me dice usted luego en tercer lugar que yo no he dicho nada nuevo le estoy diciendo dos cosas importantes la cosa es que si usted no quiere escucharlo no le da trascendencia yo sí se la doy le estoy

dos reuniones en las que el personal especializado los jefes de inspección

tenga usted un respeto institucional hacia los máximos responsables de las inspecciones tributarias

están trabajando sobre esa cuestión han tenido dos reuniones formales próximamente va haber otras

en poco tiempo entenderá que por responsabilidad institucional y por el contenido que cada una de las diputaciones y

eso forma parte del juego político y la legitimación democrática que lo que usted defiende tiene una representación y lo que nosotros defendemos

en veintisiete parlamentarios pero sobre el fondo le reitero ha habido un trabajo yo le pediría respeto le pediría confianza quizás a usted nunca le guste lo que salga de ese plan conjunto ya lo veremos también

a la interconexión a la colaboración le reitero las diputaciones forales

para que próximamente se suscriba este convenio de intercambio de información de datos tributarios y también de interconexión en tiempo real y la idea es suscribirlo como se decía en la resolución parlamentaria pues a lo largo de estos próximos

entre los tres primeros meses del año en dos mil catorce y en esa línea están trabajando

como no puede ser de otra manera para que esos objetivos

del plan conjunto de lucha contra el fraude y de la interconexión previstas en la resolución institucional se cumplan adecuadamente

actuando con mucha seriedad con mucho rigor a usted le puede parecer que no es así pero yo

y usted tendrá oportunidad de conocerlo porque el parlamento tendrá información directa porque así nos ha mandatado el parlamento que la información

y de las características del plan se transmitan a la cámara y luego nuevamente cuando

nuevamente se hará una evaluación por parte de cada una de las instituciones en sus respectivos así se está actuando en esta fase con todo respeto y con toda

de la estabilidad al crecimiento ese es el título que va a tener la conferencia o cumbre que se va a celebrar en bilbao el tres y cuatro de marzo no en cualquier otra ciudad sino en bilbao y con ese título españa de la estabilidad al crecimiento no me quedaré solo en el continente que

y tendido sino que voy a hablar también con el contenido de lo que van a decir allí

van a señalar justo aquellos que están condenando a buena parte de la población mundial pero también e incluida a la población vasca a políticas que les empobrecen

a políticas que expolian sus recursos y que hipotecan el presente y el futuro de sus hijos y de las generaciones venideras las mismas gentes que a través

están obligándonos a ver como se rebajan las prestaciones sociales a ver como se devalúa

mientras que ellos siguen acumulando ingentes cantidades de beneficio de dinero en las manos de siempre y no es un discurso genérico o un discurso

vivimos y sufrimos en euskal herria porque en este país en euskal herria tenemos una tasa de desempleo del diecisiete por ciento seis puntos más de la media de la unión europea

en términos negativos de mayor cuota de parados por españa y por grecia no es un motivo para sentirse orgullosos yo no culpo a este gobierno

en el conjunto o de toda la responsabilidad de esta tasa de desempleo tendrá la que le toque y por el tiempo desde que lleva en el gobierno pero en cualquier caso podrá convenir conmigo señor lehendakari que buena parte

de que suframos estas tasas de desempleo y de que suframos también modelos de contratación cada vez más indignos y que esclavizan a las personas por imponerles peores condiciones laborales tienen mucho que ver con las personas que se van a reunir el tres de marzo en bilbao en esa pomposa cumbre llamada de españa al crecimiento no le oculto tampoco que a nosotros no nos gusta que en esa cumbre no se vaya a hablar de todos los parados y paradas que hay en este país de las ciento setenta y seis mil personas paradas de este país de la más

que viven sin ningún tipo de prestación por desempleo porque ya la han agotado de las más de setenta y seis mil personas que están agotando ya

la radiografía que nos da la foto que nos da es que nos encontramos ante una sociedad la nuestra la sociedad vasca que va a tener que acoger

cuando lo que está viendo es que sus niveles de cobertura para tener una vida digna cada vez se estrechan más no le estoy hablando tampoco de todas las gentes que en este país en euskal herria y no estoy hablando de lugares con peor calidad de vida tienen que recurrir a los bancos de alimento no les hablo de las gentes que tienen graves problemas de alimentación

de malnutrición como ve es una foto bastante cruda y bastante dura que probablemente choque y mucho con las alfombras rojas con las visitas guiadas al guggenheim con los recibimientos amistosos o efusivos que vayan a tener estas personas no nos gusta que bilbao sea el escaparate y colaborador necesario de estas personas que han practicado y siguen practicando un expolio sistemático para seguir manteniendo un orden bipolar en el que unos pocos están arriba y la mayoría estamos abajo

en esta tribuna en este atril en muchas ocasiones y no lo critico se ha utilizado este atril esta tribuna para hacer una

a veces víctimas a veces victimarios de situaciones diversas yo

para hacer un repaso a los ilustres a la banda de ilustres una banda organizada que va a venir a bilbao y que va a ser acogida por una ciudad de este país va a venir luis de guindos

de economía y competitividad de españa antiguo responsable para españa y portugal

entidades financieras que mayor nivel de responsabilidad tienen en la usurpación de fondos de la ciudadanía de ciudadanos y ciudadanas para enriquecimiento propio y causante de esta mal llamada crisis financiera va a venir también christine

la directora gerente del fmi no voy hacer un repaso exhaustivo de todo lo que ha podido decir

diez días exigía al estado español que se armonizara la protección de los contratos temporales entre los definidos y los indefinidos pero evidentemente bajando las prestaciones y las condiciones de dignidad laboral de los contratos indefinidos

tienen peores condiciones que son los definidos

algunas como por ejemplo de hace diez días también cuando decía que destacaba el éxito de españa por lograr una salida limpia

y que tiene que seguir haciendo presión con sensaciones de más reformas para reducir el paro esta es la calaña que personas que vamos a tener en bilbado que dirían ellos también seguramente si saben pronunciarlo mejor sí y sigo sigo

este nos suena en el imaginario colectivo de todos de él hemos oído hablar mucho es el vicepresidente de la comisión europea y comisario

él mismo también decía hace unos pocos días que es importante que se continúe con la segunda fase de la reforma laboral y trate de reducir la dualidad en el mercado laboral liberalice servicios y así mejore el funcionamiento global del mercado laboral en españa es decir otra vuelta de tuerca a los intereses de los trabajadores y trabajadoras otra de las personas

diferentes ejecutivos y presidentes de entidades o macroentidades del estado español

y junto a ellos va a estar también joaquín almunia él encontrará un doble motivo de satisfacción a estar en bilbao podrá incluso ir a san mames dado que

pero nos va acompañar la misma persona y estoy hablando de joaquín almunia que se muestra extremadamente dócil con google por ejemplo y se muestra bastante inflexible

a esta persona le vamos a recibir en loor de multitudes y por ultimo que no menos importante

nos van acompañar josé manuel soria la luz del gobierno de mariano rajoy

a todos los ciudadanos y ciudadanas y como no podía ser de otra manera don mariano mariano rajoy el capo del gobierno del estado español esa misma persona en la que también ahí sí podría hablar largo y tendido y conocida es mí animadversión

pero que únicamente me quedaré en lo indigno que puede resultar acompañar a una persona que probablemente

por lo ocurrido en ceuta donde su policía su guardia civil decidió que la mejor manera de tratar a las personas porque el objetivo son las personas es disparar a los flotadores con los que intentaban huir de una muerte segura y colaborar con esa muerte segura

la foto que se va a dar es una foto de escarnio y es una foto que se parece menos a ese tribunal de sabios o a ese foro de relanzamiento que se pretende y que en todo caso y perdónenme la dureza de estas palabras se parece más a la foto del tribunal de nuremberg y ojalá con los años sea ese su destino

hay que reaccionar porque no nos sirve que se pueda utilizar a este gobierno a este país para lo que el propio

que había que defender este foro como un ejemplo de colaboración institucional y de participación común de las instituciones al frentismo catalán yo no creo que este gobierno quiera ponerse frente

participando de esta realidad lo están haciendo porque ese es el interés

y por eso hablaba del continente por eso han decidido hacerlo aquí quizás como un nuevo pago a las provincias traidoras se les va a poner una alfombra roja a quienes pisotean nuestros derechos y se dice que todo vale para posicionar a bilbao supongo que convendrán conmigo en que no todo vale para posicionar a bilbao

no es la mejor manera de posicionar a bilbao que apoyar a quienes nos imponen reformas laborales y condiciones de déficit que nos empobrecen no vale para apoyar a bilbao y eso lo ha dicho esta cámara por eso entendemos que hay una falta de respeto y consideración participando de esta realidad y lo que le pedimos al lehendakari es que nos señale cuál es el objetivo que pretende este gobierno vasco participando y dando cobertura

si bien es cierto señor matute que la cumbre económica se celebrará en bilbao el gobierno vasco no ha participado directamente en la organización de la misma

me planteó personalmente esta iniciativa y me invitó a tomar parte en el acto de apertura de la misma este foro

en colaboración con el club de exportadores e inversores y cuenta con un panel de participantes de primer nivel no seré yo quien entre en las disquisiciones

el objetivo de esta cumbre económica que se celebra en bilbao es impulsar un modelo de crecimiento económico basado en la eficiencia la competitividad y la internacionalización y comparto la necesidad de impulsar un nuevo modelo de crecimiento comparto también

en la empresa y desde luego creo que el reto de nuestra economía es la internacionalización un objetivo de largo aliento que considero un reto de país

objetivos como lo están también el conjunto de las empresas de nuestro país todas las empresas pequeñas

desde estas mismas claves y estoy convencido de que se van a sentir interesadas por las propuestas e ideas que se planteen

eta esportatzeko me ha interpelado usted por los objetivos del gobierno vasco ante esta cumbre le he citado tres que considero importantes

con la que afrontamos este encuentro sin otros juicios de valor primero acoger a las personas e instituciones participantes nos mueve el interés de darnos a conocer en el mundo y estos eventos internacionales contribuyen a este objetivo de país queremos que euskadi sea un referente internacional queremos demostrar que somos un país abierto y acogedor un país con capacidad

es escuchar tenemos mucho que aprender en competitividad y en internacionalización las empresas y las instituciones tenemos que escuchar para mejorar

aceptar que nos interesa conocer a personas de gran experiencia y trayectoria me consta el interés de muchas personas que quieren acudir a este encuentro

extraer conclusiones y aprender por lo tanto incluso de lo que en nuestro modelo económico vasco podemos y no podemos hacer o es aconsejable o no

y el tercer objetivo es compartir del encuentro nacen las oportunidades la internacionalización es una clave de desarrollo para nuestras empresas

somos un país pequeño y necesitamos aliados para nuestros proyectos y este foro es una oportunidad porque se presentan proyectos de gran recorrido en el exterior insisto sin juicios de valor para las personas que usted ha mencionado o lo que puedan representar arrera egitea entzutea eta partekatzea

económicos de un nuevo modelo económico alternativo bien

el modelo económico vasco sigue avanzando y es el que yo estoy dispuesto a defender esta cumbre es una oportunidad para escuchar y también para dar a conocer nuestro propio modelo y en mi intervención presentaré las claves del modelo económico vasco está recogido en nuestro proyecto de política económica con estas diez prioridades siguientes

innovación y emprendimiento apuesta por la internacionalización financiación a la empresa y los proyectos generadores de empleo capacitación de las personas concertación social sistema de ciencia tecnología e innovación orientado a la empresa

fiscalidad para el empleo la competitividad y la sostenibilidad del modelo social y sector público eficiente y capaz de liberar la reactivación económica diez prioridades de la reactivación económica y el empleo hau da gure eredua

hay dos partes en su respuesta la que tiene que ver casi con los valores con la voluntad de darles una buena acogida y los no prejuicios y escuchar y el compartir y una en la que va a desarrollarles a lo largo de la jornada

los éxitos o las líneas de trabajo del modelo vasco

y con luis de guindos para poder explicarlo es decir algo así como ocho minutos para explicarles el milagro vasco

poderosos mentalmente e intelectualmente quizás en ocho minutos sean capaces de decodificar

parece que ese no va a ser el objetivo y no digo que no pueda estar mucho tiempo hablando de lo que usted y su gobierno entiende que tiene que ser

lo que estoy diciendo es que ustedes no tienen esa función en esas jornadas no la tienen

con iñaki azkuna y luis de guindos veinticinco minutos de los cuales le tocan ocho no parece

no lo vamos a poder hacer nosotros que evidentemente no vamos a estar ahí sino que vamos a estar fuera en todo caso porque también de la misma manera que a usted le consta que muchas personas quieren participar para aprender

quieren estar para emprender para emprenderla a gritos en este caso probablemente y voces de protesta contra todo lo que nos están imponiendo porque no es cierto

desde luego no en aquello que sea tan deseable no todo vale usted nos está planteando aquí una alianza con el mismo diablo para poder aprender

se me ocurren mil maneras y seguramente algunas muy poco decorosas para poder situar a bilbao en la centralidad del mundo mundial pero seguramente ustedes

estaría de acuerdo en que cualquier cosa no es buena para situar a bilbao en esa centralidad mundial y menos si es impuesta y menos

a una vocación clara del partido popular por situar a este país dentro de una realidad bastante opresora y bastante deprimente como es la del estado español y bastante ruin

del estado español se habla de compartir de compartir con quién con aquellos que intermon oxfam dice

las instituciones del estado han sido secuestradas por las élites y los poderes económicos

marginando al ciudadano de las decisiones políticas y degradando el sistema democrático el que tendría que proteger esta cámara que de seguir así

de poder eso es lo que están haciendo estas personas y estas son las personas de las que queremos aprender con las que queremos compartir y a las que les vamos a dar la bienvenida sinceramente a mí me parece que a estas personas como banda

y nosotros hemos decidido prestarles el palacio guggenheim para que puedan

y mediante protestas y movilizaciones por las decenas de miles de personas que sufren de manera directa sus condiciones y que también recuerdo son vascos y vascas y que también quieren aprender

pero lo quieren desde abajo y lo quieren sufriendo las consecuencias directas de las políticas

en sus palacios de cristal va a llevar a cabo por eso le pedimos que no participe de esa realidad porque esa realidad no es una oportunidad es un insulto

da que hablar teniendo en cuenta lo que pasó en gasteiz hace unas escasas décadas y lo que pasó además con trabajadores la elección de la fecha es desde luego curiosa es un castigo porque esa decisión nos parece más un castigo contra las provincias traidoras como le decía en su momento que otra cosa y es un menosprecio y es un menosprecio a este parlamento

las personas que van a intervenir en este simposium este parlamento se ha posicionado contra la ley de seguridad ciudadana que a buen seguro se intentará imponer

o que se la están intentando por lo menos porque no se van a dejar es en definitiva un reproche general a lo que en este país debemos hacer de forma democrática por eso

cargada de una caricaturización de juicios de valor de una

le reitero señor matute cuáles son los tres objetivos además de las diez prioridades que yo estoy interesado en manifestar y no solamente en lo que pueda ser

tres objetivos como son acoger escuchar y compartir es sencillo

que tenemos mucho que escuchar mucho que aprender y mucho que mejorar sí señor matute mucho que mejorar y se lo reconozco

muchas personas van a acudir a esta cumbre con este mismo objetivo y le invito también a usted le invito también a usted a que participe a que escuche a que no participe desde el otro lado de la barrera sino a que participe en la jornada ustedes hablan de un modelo económico alternativo todavía

mire cuentan ustedes con medios y con recursos suficientes para ponerlo en práctica pero todavía no lo han hecho eso sí conocemos su anti modelo la oposición al actual modelo económico vasco

que son ustedes modélicos pero a la hora de llevar a la práctica su alternativa todavía veo que no han avanzado

y también para ustedes por lo tanto puede ser de interés acudir a esta cumbre económica aplicar una actitud positiva poner en práctica la capacidad de escucha

yo les invito insisto a participar a acoger a escuchar y compartir y a dejarnos de juicios de valor porque usted ha hablado

podríamos hablar de procesos procesos en los que incluso se juzgó

que conculcaron todos y cada uno de los derechos humanos y en especial el fundamental el derecho a la vida lo mejor que podríamos hacer todos es tomar nota

buenos días señor lehendakari estará de acuerdo conmigo y sé que lo está porque lo ha dicho antes que siempre es importante que una ciudad vasca en este caso bilbao sede de un evento internacional de la repercusión de la eurocopa este evento es una buena oportunidad para los intereses de los vascos para nuestra imagen y proyección internacional y más importante lo es aún en un contexto económico como el actual

y de negocio para atraer visitantes que consuman que vayan a nuestros hoteles

por ello un objetivo prioritario de todas las instituciones implicadas debiera ser precisamente el trabajar para aumentar las posibilidades de que bilbao sea la sede de la eurocopa en el año dos mil veinte

pelear por hacer ver las potencialidades de bilbao lo que hace es lo contrario dinamitarlas y no contento con dinamitarlas una vez lo reitera

irresponsables y poco serias como provincianas señalando que si españa jugaba en san mames prefería que la eurocopa no se celebrara en bilbao

pero con la boca pequeña porque al día siguientedio el golpe de gracia dinamitando con más profusión las posibilidades de bilbao

habrá un problema de orden público y de seguridad ciudadana esto

por eso yo le pregunto señor lehendakari comparte usted las declaraciones del señor bilbao porque con esa ambigüedad calculada que forma parte del adn del partido nacionalista vasco usted ni sí ni no sino todo lo contrario

como sede de la eurocopa para que jugase la selección de euskadi eso quiere decir señor lehendakari que prefiere privar a los vascos de un proyecto que pueda generar riqueza y proyección internacional si eso supone que la roja y no euskadi va a jugar en san mames

que su gobierno que es responsable de la seguridad en euskadi no va a ser capaz de controlar ese problema y va a tener que sacar las tanquetas a la calle como dijo el señor bilbao y qué es para usted un problema de orden público señor urkullu qué quiere decir es perturbar el orden público que los que nos sentimos vascos y españoles lo expresemos en la calle

que una parte de los ciudadanos de euskadi no puedan apoyar a la roja no pueden expresar lo que piensan porque de hacerlo así estarían generando un problema de orden público por eso

usted que tiene la obligación de trabajar y pelear porque proyectos que sean capaces de generar riqueza en euskadi y evidentemente ser la sede de la eurocopa lo es qué pasos tiene previsto dar para mantener vivas las opciones de san mames

y de esa forma restar el efecto de las desafortunadas declaraciones del señor bilbao nada más muchas gracias

reitero lo que he dicho en mi intervención anterior sobre este mismo tema todas las instituciones que formamos parte de la sociedad san mames barria hemos dado los pasos que eran necesarios hasta el momento

compartimos un mismo propósito y hemos dado juntos todos los pasos

hasta la fecha el resultado ha sido el deseado porque las cuatro ciudades presentadas

el mes de diciembre pasado hace dos meses dimos otro paso nombramos a la persona responsable de la candidatura de bilbao el director general del athletic club y lo hicimos también con el acuerdo de todas las instituciones públicas y respondo a su pregunta concreta el siguiente paso lo haremos a partir del día veinticinco de abril la candidatura de bilbao elaborará y presentará los informes para el proceso de evaluación

le garantizo señora llanos que volveremos a dar este paso con el respaldo de todas las instituciones eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

usted habla de las instituciones y habla de los pasos de las instituciones pero usted como yo sabe que las declaraciones son muy importantes y que las declaraciones en muchísimas ocasiones pesan tanto o más que los hechos a la hora de decidirse por una ciudad y resulta descorazonador que quienes tienen la obligación de preocuparse por hacer valer nuestras posibilidades

para traer proyectos a nivel internacional lejos de hacerlo se queden en ese provincianismo trasnochado en ese mirarse yo comprendo que para usted es difícil contradecir las afirmaciones de otro líder de su partido pero usted hoy aquí debería de garantizar que no va a haber ningún problema de orden público que no va a importar que españa

la eurocopa tiene que venir a bilbao bilbao tiene que ser esa sede porque eso es ser un político

provincianismo trasnochado y mirarse al ombligo nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzuteko lehendakari jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señora llanos vamos a lo serio

yo defiendo bilbao como sede de la eurocopa lo defiendo como lehendakari

y defiendo también la oficialidad de la selección vasca de fútbol y antes en mi intervención inicial he puesto en potencial en condicional si pudiera participar

en la eurocopa del año dos mil veinte yo no sé por qué tiene esta seguridad usted en todo caso este proyecto lo estamos llevando a cabo y lo vamos a seguir desarrollando señora llanos desde la colaboración y el acuerdo de todas las instituciones públicas lo importante

y el próximo hecho es la presentación del informe bilbao señora llanos vamos a responder a los requisitos de organización financieros comerciales y de infraestructuras en los requisitos exigidos para que bilbao siga siendo

de sede de la eurocopa dos mil veinte y reitero que este informe lo redactaremos en el seno de la sociedad san mamés berria con la participación de todas las instituciones públicas lo he dicho con anterioridad y lo reitero todas

somos partícipes del mismo objetivo y vamos a trabajar para conseguirlo y antes me he referido y ahora también insisto en el ejemplo del mundial de basket

las mismas instituciones trabajando juntas hemos podido conseguir el objetivo deseado y este logro merece un reconocimiento hemos trabajado de común acuerdo

las instituciones hemos acreditado un saber hacer y los logros alcanzados creo que son merecedores de un margen de confianza y confío señora llanos confío plenamente en el ayuntamiento de bilbao en la diputación foral de bizkaia

y el athletic club trabajando juntos en orden a ese objetivo de bilbao sede de la eurocopa dos mil veinte eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

presidenta señorías lehendakari en san sebastián en el municipio de san sebastián una minoría

en igeldo sobre un espacio compartido que es todo el territorio de san sebastián ha decidido unilateralmente ejercer

ejercer una visión de la autodeterminación un sentido de la independencia de ese territorio y eso se ha hecho en un país del que usted preside donde usted es la máxima autoridad política

ver cómo se trocea en ausencia de las reglas legitimas de la democracia o cómo se pretende trocear unilateralmente y por una minoría un territorio por esta razón nuestro grupo tiene mucho interés en saber cuál es su posición porque creo que estamos ante un ensayo muy peligroso

de hecho estamos actuando política y jurídicamente para intentar evitarlo

que aceptó la desanexión de una de sus partes iurreta he conocido bien estos dos procesos y he participado en ambos se pusieron en marcha de manera acordada se analizaron los procedimientos jurídicos institucionales se crearon las comisiones mixtas

se realizaron y analizaron los estudios jurídicos y económicos necesarios ambos procesos fueron aceptados por ambas partes y redundaron en un beneficio mutuo con conocimiento de causa puedo decirle también que el proceso de igeldo es solo un proceso de desanexión ni más ni menos

no comparto en absoluto que se trate de un ensayo a pequeña escala de la reivindicación del derecho a decidir como alguien afirma si se ha planteado en ese sentido ha sido por el interés exclusivo de bildu el problema de igeldo es que bildu ha llevado el proceso contraviniendo

segundo los informes jurídicos realizados por los propios servicios internos

cuarto los informes jurídicos de este mismo ayuntamiento y quinto desoyendo las recomendaciones del informe económico solicitado por el propio ayuntamiento en relación a este tema a partir de aquí bildu ha pretendido desviar la atención y siento decirle

desde lo que haya sido la estrategia de bildu por mi parte quiero mostrar mi compromiso con el cumplimiento leal del ordenamiento jurídico regulador de los procesos de desanexión municipal y también con los procedimientos para autorizarlos desde la negociación y el acuerdo eskerrik asko

lehendakari intentaré ayudarle a que entienda por qué le hago esta pregunta porque efectivamente como ya se he señalado este es su ensayo a escala una escala pequeña pero es un ensayo a escala de a dónde lleva el derecho a decidir

una reivindicación lo que significa inventarse unas reglas de juego en medio del proceso para que uno llegue a poder cumplir con sus objetivos

está contemplado en nuestras competencias forales hay un procedimiento

en este momento de una forma práctica como es una parte en igeldo y otros usan de momento de manera teórica pero que hablan exactamente en los mismos términos en ese derecho a decidir

es decir en ese raca raca claro al final ese tipo de políticas

con aspiración a que sea en escala mayor lleva a que ustedes y nosotros estemos trabajando en este caso concreto con argumentos como los siguientes décimos que carece de apoyo de elementos históricos lo que se está haciendo en igeldo

económicamente que tiene una autofinanciación muy limitada y que por lo tanto no tiene

identidad costumbres personalidad no es determinante esta fórmula ni constituye motivo de interés público se plantea que tropieza con dificultades legales que invalidan el objetivo que no se dan circunstancias de legalidad sobrevenida

que la voluntad por sí sola expresada en condiciones

no es suficiente para obtener la segregación territorial que no se podían atender los servicios actuales me imagino que todo esto le suena de algo

que la independencia expresada como se expresa en términos nacionalistas no deja de ser una chapuza y yo creo que este parlamento es un lugar muy visible y muy adecuado para poder analizar y reflexionar sobre este tipo de cosas los espacios compartidos

la política en común hay que hacerla en común acuerdo y hay que hacerla con las reglas de juego de la democracia no se puede hacer con tirones y con jirones unilaterales cuando esto se hace efectivamente nos encontramos con que ustedes tienen que abandonar un cierto ideario nacionalista para poner orden en un territorio que pretende
dividir una minoría efectivamente el futuro está más por flandes que por los nacionalismos radicales eskerrik asko prieto jauna

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor prieto de la misma manera que a mí me suena efectivamente

espero que a usted también le suenen planteamientos como el de la consulta legal y pactada tras acuerdo en las instituciones y ratificado por la sociedad espero que le suene

sin dar ninguna oportunidad a la negociación y el acuerdo de una forma

sin atender a ningún tipo de razón jurídica institucional o económica se lo he dicho también en mi primera respuesta se ha desoído a las juntas generales se ha desoído al ayuntamiento y al resto de partidos como si estos no representarán la soberanía popular y ante la falta del mínimo acuerdo consenso y para tratar de eludir la responsabilidad bildu

que con el referéndum que se va a celebrar de forma acordada y legal en escocia para bildu igeldo es como escocia pero tal y como es este ejemplo

el ejemplo es que para bildu tal y como se ha demostrado esta semana insisto

insisto este ha sido un planteamiento interesado y mi valoración señor prieto es que me va a permitir no participar en este ardid interesado y urdido por la izquierda abertzale desde el conocimiento de causa

a las juntas generales de gipuzkoa y a las decisiones que al respecto puedan adoptar incluidas las propuestas de actualización acordada

buenos días lehendakari con independencia de que me vaya a contestar usted o no

doy por supuesto que para estas alturas usted conoce perfectamente el asunto del que vamos a tratar ahora lo contrario me parecería impropio de su cargo y además no permitiría que usted comprenda el alcance de lo que le voy a preguntar porque a pesar de que la pregunta es muy explícita

a añadir motivaciones políticas esto es algo más que una certidumbre porque la sentencia de la que habla nuestra pregunta declara que ese trabajador que mencionamos

pero que se le abonarán sus retribuciones y sin embargo no

usted cree señor lehendakari que en la situación en la que estamos

se puede tener durante todo ese tiempo a una persona sin prestar los servicios sin realizar su trabajo

cobrando por ello porque nosotros no pedimos canonjías ni sine curas pedimos el derecho al trabajo y pedimos que se restituya a su servicio al trabajador que

sin causa alguna para ello acudiendo a la ley de la jurisdicción social se le manda a casa pero esa práctica es idéntica aunque no tenga respaldo legal al acoso o al mobbing por lo tanto le pregunto usted cree que en esta situación

bai eskerrik asko mahaiburu andrea señor bixen itxaso hay que leer la sentencia completa

de lo actuado no resulta que el despido sea una construcción artificiosa destinada a encubrir una represalia contra el trabajador por su ideología

no es responsable ni le son en definitiva imputables pero que cabe de calificar como causantes de un conflicto en el ámbito empresarial por consiguiente el despido no

para represaliar al actor ni su adscripción política o sindical influye en el mismo sino que se basa en unos hechos verdaderamente acaecidos si bien de los que no cabe responder al demandante ante esta sentencia

decide optar por la readmisión entre las dos opciones que daba la sentencia plantea

optar por la readmisión y por la interposición de un recurso de suplicación
y esto es algo que está también contemplado por la legislación vigente besterik ez eskerrik asko oregi andrea itxaso jauna zurea da hitza

es verdad yo me he leído la sentencia completa y dice eso mismo pero verá los elementos de convicción que se forma la jurisdicción son distintos a los que se forma en un ámbito político como es este verá lo que se llama en el proceso penal pieza de convicción tiene unos elementos tasados pero aquí en el ámbito de la política son de otra naturaleza y cuando décimos en nuestra justificación que este no es el caso único esto que no es el boletín oficial del partido socialista dice que hasta un juez aprecia en otro asunto motivaciones políticas en un despido es decir esto empieza a ser algo

que creo que compartirá con nosotros los socialistas que lleva a la política a unos terrenos poco deseables poco deseables

ustedes que están tratando de alumbrar un tiempo nuevo en el autogobierno nos plantea dudas sobre si estas cosas que suceden hoy qué pueden suceder en esos tiempos que nos anuncian

realmente cuando a un trabajador se le despide sin causa y se le lleva arrinconar a su casa

hoy aquí presente cuando tendría que estar prestando sus servicios

y hay un recurso pendiente del cual hablaremos tendremos ocasión de hablar en el futuro al que ustedes fían

y en cambio ese trabajador por tanto está parado en casa recibiendo una retribución que no le correspondería por no prestar servicios le corresponde por derecho yo lo que le digo señor lehendakari

queremos saber que ese compromiso es con todas las personas no solo con determinadas personas también con nosotros y usted esto no es un trámite de ruegos y preguntas pero esta pregunta lleva a un ruego puede revertir esta situación no permita que estas situaciones se prolonguen por más tiempo porque saben que no nos conducen a un terreno edificante en lo político

señor itxaso es importante decirlo todo y no solamente trozos

de suplicación como hemos dicho antes ante el tribunal superior de justicia del país vasco por lo que la sentencia no es firme dado que en la fecha de la opción el trabajador se encontraba en situación de incapacidad transitoria

contempla esta posibilidad se decide readmitirle y eximirle de la obligación de prestar sus servicios hasta que se resuelva el recurso de suplicación las razones que motivan

resuelva el recurso de suplicación son estrictamente laborales y más concretamente relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el deber de vigilancia de la salud cuando la actual dirección opta por la readmisión de este trabajador en las mismas condiciones que ostentaba este continua en la situación de incapacidad transitoria

con un estado de salud preocupante relacionado con su anterior desempeño laboral si la sentencia se confirma y adquiere firmeza

evidentemente mientras tanto la decisión adoptada garantiza los derechos del trabajador derivados de la sentencia protege su salud

seguridad jurídica hasta la resolución del recurso eskerrik asko eskerrik asko

que creo no debería tener que hacérsela por qué no quiere usted recibir al alcalde de barakaldo

poco tiempo después de ser nombrado alcalde de la cuarta ciudad de euskadi

un contacto institucional con quien ostenta la más alta institución de euskadi así que con naturalidad

muy amable que lógicamente él firma en ella el alcalde valoraba la lealtad institucional

entre las administraciones a las que ambos representan además

y que le gustaría abordar con usted pero usted se niega a recibirle y

ella le comunica esa decisión mediante una carta de corte administrativo que a mí

al leerla me sugiere la imagen del alcalde ante una ventanilla angosta de la que es despedido con un tonillo de suficiencia propio de un lenguaje funcionarial

que se ha equivocado de ventanilla y le derivan a siete departamentos sin indicar siquiera a quién deberá dirigirse en cada uno de ellos

ese despachar la negativa con cierta desconsideración sobre todo a un alcalde de una ciudad cabeza de la margen izquierda

que necesita una actuación especial de los poderes públicos fíjese usted si no hay temas y perspectiva global para hablar por eso el alcalde le proponía hablar de asuntos relacionados con la promoción económica y el empleo o de la vivienda

además lehendakari un alcalde está revestido de la representatividad más próxima al ciudadano y a la vez representa a todos los habitantes de su municipio no se me ocurre una representación más próxima a la gente entonces cómo puede ostentar

sin cumplir con el acogimiento y el respeto a la institución de alcalde es que no lo entiendo cómo puede negarse

si al final es la mejor tarjeta de visita para usted en barakaldo seguro que a cualquier persona

que el lehendakari y su alcalde se encuentran a mí no se me ocurre mejor imagen para transmitir la validez y la valía de las instituciones y de la política

lo tenía muy fácil podía haberlo recibido como cortesía institucional

encaminarle a los consejeros que correspondiera para asuntos concretos en cualquier caso es un asunto que tiene muy fácil solución
comprométase hoy aquí a recibirle y ya está está ahí arriba puede escucharle gracias eskerrik asko

señor reyes y señor alfonso garcía alcalde de barakaldo con todo el respeto es cierto señor reyes

un listado con las cuestiones que proponía abordar en esa entrevista

como afirma usted en la formulación de su pregunta en ningún momento he negado una reunión al alcalde de barakaldo eso no es cierto y le pido señor reyes que lo retire

todo lo contrario atendí con interés la solicitud recibida entendí que era tal la relación de temas

sobre las que el gobierno vasco sea competente únicamente o de si afectan únicamente a barakaldo algunas de las cuestiones o si estaban tratadas en otros ámbitos como lo están algunas de las cuestiones contempladas también en acuerdos alcanzados incluso con el partido socialista de euskadi sin esperar a cuestiones de agenda pensé en la eficacia de la actuación y para mí señor reyes y señor garcía la misma importancia tiene barakaldo que cualquier otra ciudad cualquier otro municipio

dar cauce de resolución práctica a todas las cuestiones solicitadas el alcalde como digo me hizo llegar una relación de diecinueve cuestiones a tratar y después de que lo primero que hice fue analizarlas para a continuación

en las materias planteadas como usted ha dicho señor reyes son siete los departamentos del gobierno que han recibido la información relativa

del alcalde de barakaldo todos los departamentos están a su disposición para avanzar en lo que pueda ser el tratamiento y resoluciones de las cuestiones planteadas

esto es lo importante la operatividad y la eficiencia y no tengo ningún problema señor reyes no tengo ningún problema señor garcía en recibirle diecinueve temas sobre los que he mostrado lo que pueda ser la interpretación de qué somos competentes quiénes son otras instituciones etcétera

le agradezco la respuesta me parece constructiva y yo esperaba otra cosa con lo cual

retirar que usted ha negado la entrevista porque cuando alguien manda una carta para que alguien la reciba y le derivan a otra persona es que no le recibe

me parece un gran acierto y por cuestiones sectoriales un ejemplo nada más

a los tres obispos vascos para tratar expresamente de un conflicto que tenían en kristau eskola entre otros asuntos deia suele acertar bastante bien con los contenidos de las entrevistas del pnv

al departamento de educación pero eso no importa quiero decir que si usted

yo creo que está cumplida la intención de mi pregunta gracias eskerrik asko reyes jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor reyes le pediría que el ejemplo de la recepción a los obispos también lo retire usted

y si usted hace referencia a lo que son informaciones publicadas y las vincula con el partido nacionalista vasco vincúlelas con el partido nacionalista vasco pero no con el lehendakari que fue quien estuvo reunido con los obispos y no solamente para esa cuestión que usted plantea en todo caso

previas realizadas le indicábamos la relación de los departamentos responsables

ese es el procedimiento que entendí que ante los diecinueve temas diecinueve temas señor reyes entendí que permite avanzar en lo importante en tratar de resolver las cuestiones de hecho insisto creo que se ha avanzado ya en algunas de las materias sinceramente señor reyes no llego a comprender dónde se encuentra el problema salvo que entendamos

de cortesía una reunión protocolaria una reunión incluso para tratar temas pero entenderá usted también que si yo tengo que ante lo que pueda ser una batería de diecinueve temas

creo que es mucho más operativo desviarlo a lo que pueda ser la atención directa y operativa y efectiva

las cuestiones planteadas por el alcalde y yo también eskerrik asko lehendakari jauna